pues feliz año nuevo urte berri on a todos es la primera oportunidad que tengo yo de hablar en este parlamento este año que además es una buena manera al menos para mí de comenzar el año porque al venir a defender

que me gusta porque tiene su parte reivindicativa y me resulta muy agradable

abstenerse y además significa traer al pleno de la representación de los y las ciudadanas vascas un asunto del que poco se habla

para nuestro sector primario y por lo tanto para nuestro país para euskadi porque yo siempre he mantenido mantengo

que un país que esté convencido de que lo es debe cuidar con prioridad absoluta

su proveedor de alimentos hoy parece y en cierta medida es cierto que cualquier alimento se puede obtener

sin necesidad si quiera de tener propiamente una agricultura y eso es cierto

pero siento esto verdad a día de hoy nadie puede garantizar que lo sea en un futuro

por ello y ante eventuales que no ficticias situaciones indeseables

y capacidad productora de sus alimentos además de mantener un mundo rural todos ellos imprescindibles para nuestra supervivencia pero no solo eso la agricultura es un sector estratégico que estructura un país no solo como complemento imprescindible de las economías industriales comerciales terciarias sino que efectúa un imprescindible papel en el mantenimiento del territorio

y alguien podrá preguntarse a qué viene esta soflama en defensa de la agricultura en general si veníamos a hablar de una actividad familiar pues por eso

de agricultura familiar porque euskadi tiene una orografía una estructura de las explotaciones y una tradición que las hace como pensadas por nuestros ancestros

gestionada y operada por una familia incluyendo tanto a mujeres como hombres

si bien el año internacional de la agricultura familiar y aquí voy a intentar explicar una cierta contradicción que se ha venido a explicar aquí es del dos mil catorce

pero hay alguna contradicción en que una actualidad explicada el dos mil catorce siga vigente el dos mil quince que lo sigue y sigamos defendiendo lo que se dijo el dos mil catorce que sigue vigente el dos mil quince y seguramente el dos mil catorce va a seguir vigente pues venimos a

porque este año sigue vigente también es cierto que hubiera sido mucho mejor

de transmitir a la globalidad de la sociedad la necesidad de apoyar este tipo de agricultura el hecho de haber hecho una declaración institucional del parlamento pero no fue posible y puedo decirles que no porque nuestro grupo y el proponente de esta pnl le pusiéramos empeño que le pusimos

o upyd se opusieran a la misma que no se opusieron deduzcan

pero hoy estamos aquí para rectificarla aunque lleguemos algo tarde y el método utilizado no sea el óptimo que aquí estamos para visualizar nuestro apoyo a la agricultura familiar en euskadi

porque aquí además parece que una empresa como kaiku ubicada en este país solo por el hecho de que

yo le invito a que lea de verdad los proyectos de esa empresa que a mí no me toca defenderla para nada

y aprenda lo que está haciendo a ver si ya vale

ya es nefasta para el medio ambiente para la salud y la economía de nuestro país venimos

de que los impulsores no del documento sino del propio año internacional son gentes de euskadi que de una manera callada vienen trabajando

organizada por el foro rural mundial con sede en arkaute y en gasteiz en euskadi

para este año internacional invito a leer las conclusiones de aquella conferencia que es un verdadero manifiesto en defensa de la agricultura familiar la onu

que se celebrara a lo largo de todo el año dos mil catorce ese año el propio foro rural ha sido nominado por la fao responsable del programa de la sociedad civil para el año internacional estamos hablando por tanto

con múltiples actos institucionales y declaraciones de interés y una de estas

podamos aprobar donde aparecen cosas como el derecho de los países y de los pueblos a hacer sus propios alimentos y un apoyo mayor a la agroecología que jamás mi grupo parlamentario se ha negado a apoyar jamás no hay ninguna contradicción

y empiezo a terminar igual que he empezado para nosotros es imprescindible mantener la actividad agraria nuestro sentido del país nos lo exige y dentro de sus múltiples formatos

y no solo porque es la mejor manera de mantener una agricultura viva territorialmente equilibradora socialmente humana y medio ambientalmente sostenible

y voy a terminar con la frase que fue el eslogan del año internacional y que contiene en muy pocas palabras todo un mundo de ideas y de intenciones y si alguien quiere encontrar una contradicción

que venga aquí y que intente explicarla la frase es agricultura familiar cuidar el mundo

que van a apoyar esta iniciativa y decir que nos han parecido en el grupo popular muy pobres los argumentos apara oponerse iniciativa porque ha buscado ha pretendido buscar unas contradicciones en algo que nunca nunca se han dado en esta cámara por lo menos por nuestro grupo ni tampoco por la portavoz yo procedo del mundo agrícola

a la agricultura produciendo producto local

tal vez es que no tiene más argumentos para oponerse que eso es lo que ha quedado en evidencia argumentos para oponerse el noventa y seis por ciento de los productores del país vasco son agricultores

de que nos habla usted de que porcentaje nos habla usted

es en contra bueno usted representa a un porcentaje mínimo del sector agrícola del país vasco
eso es lo que ha quedado en evidencia nada más y muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz andrea

sí presidenta el grupo socialista

porque tenemos en nuestras manos una oportunidad única para impulsar la agricultura familiar

no es solo la subsistencia las familias en situación de necesidad sino que nos parece que es un espacio de seguridad alimentaría asociativa y llena de oportunidades para un derecho rural inclusivo reclamamos más movimientos para conseguir mejores políticas agrarias y mejorar en el derecho a la tierra prioritariamente

lo mismo que el mar la pesca artesanal o para los pastores

unos años con voluntad integradora con las aspiraciones de que se mejoren las condiciones de vida ya que sufren dificultades en el acceso a precios asequibles para hacer frente a la compra de tierras agua pastos semillas

equipos de trabajo todo lo necesario para desarrollar su trabajo el envejecimiento de la población algo que nos preocupa

explotaciones agrarias nos parece de vital importancia el reconocimiento efectivo y real del papel de la mujer agricultora

como parte esencial de una regulación jurídica adecuada

una gran preocupación por la escasa o nula participación de los pequeños agricultores y pescadores en los procesos de toma de decisiones y de

y de forma muy particular en la fijación y evolución de los precios de sus productos en la cadena de distribución

la volatilidad de los precios sometidos en muchas ocasiones a intereses especulativos

en la agricultura familiar e impacto de los efectos adversos del cambio climático que afecta al sistema agrícola

aumentando el riesgo de plagas y patógenos que se protegen a través de las explotaciones agrícolas se debe y debemos trabajar con intercambios profesionales y científicos para poder trabajar en investigación como ayuda a contrarrestar el cambio climático en la agricultura

fauna flora rural marina que provocan los marcos cultivos intensivos y que privan a los países afectados de

otro problema añadido que va a repercutir en la agricultura familiar es la reforma de la pac

que se encuentran con unas decisiones ya tomadas absolutamente decepcionantes están sufriendo un deterioro progresivo

se debe garantizar la existencia de una agricultura familiar eficaz sostenible

para alcanzar un modelo de desarrollo generacional y equitativo de los espacios rurales urbanos y marinos
muchas gracias eskerrik asko fresno andrea

bueno usted mide el interés interés es traerlo y apoyarlo o no apoyarlo pero es traerlo usted

haberlo traído especificando haber hecho una enmienda especificando cosas usted no ha trabajado que ni ha hecho una enmienda y

una crítica genérica del gobierno vasco que siempre ha apoyado a las multinacionales a las grandes agriculturas traiga datos

de la comisión de agricultura está hecha básicamente con apoyo y con informes hechos en el gobierno vasco en el departamento de agricultura

es una reforma que intenta en un momento determinado en toda europa apoyar básicamente la agricultura familiar le invito a que lea los dos planes estratégicos rurales vascos apoyados en este parlamento y aprobados en este parlamento a ver de qué está hablando los dos planes estratégicos rurales vascos cuando usted venga aquí

quiero informes quiero decretos que digan

y las normas que no estamos haciendo reparto de la riqueza en agricultura no no hemos venido aquí a hacer un reparto

a apoyar un manifiesto en defensa de la agricultura familiar y que lo que estamos intentando es aumentar la propiedad de las tierras tráigame datos es que no no no sé a qué ha venido aquí yo le puedo decir que en esencia la mayor parte hoy en día de la política agraria que se hace desde la administración

en euskadi está firmada por los responsables institucionales del gobierno y de las tres diputaciones forales diputación foral de gipuzkoa incluida esa es

qué apoya ese pdr si apoya la agricultura familiar o no y olvídese de las multinacionales

reducción radical de los ingresos reales de la plantilla en su apuesta por la retribución variable en función de ventas en la práctica posibilidad de que las empresas apliquen o no subidas de forma arbitraria hau da soldatak igo edo jaitsiko dira

aumento de la jornada laboral en veintiocho horas anuales pasando de mil setecientos setenta a mil setecientos noventa y ocho horas

domingos y festivos ataca de lleno a la conciliación de la vida laboral y personal o familiar ez dago esan beharrik lan baldintza

la iniciativa que nos trae hoy bildu es una iniciativa con la que en esencia estaríamos de acuerdo

negociaciones y como fruto de las mismas aboquen en convenios

sobra decir que estamos de acuerdo lo que pasa señora arrondo que usted ya en la justificación que precede a la parte propositiva nos plantea que efectivamente esto

estando de acuerdo en el propósito general de mejorar las condiciones de los trabajadores vascos sean del sector del comercio o de cualquier otro sector de actividad económica nos encontramos con el mentado sindicato

hace apelación a la negociación colectiva y claro resulta que todo eso

incluso con sus propios postulados en los que ha defendido

la negociación empresa por empresa a tal punto que el informe que realiza el consejo de relaciones laborales cada dos años el último lo hizo el año pasado por estas fechas hablaba de el ejercicio dos mil trece

de empresa han aumentado de una manera notable y efectivamente la negociación colectiva por sector

al punto de que solamente un cuarenta por ciento de los trabajadores vascos tiene en este momento cobertura

luego hay algunas cuestiones de carácter o de naturaleza semántica que no tienen mayor importancia porque cada uno sabe cómo se expresa y cómo quieren llamarlo pero cuando hablan del ámbito vasco

pero convendrán con nosotros en que el ámbito vasco excede de lo que es el ámbito autonómico que es sobre el que estamos tratando y por supuesto el ámbito vasco

expresado en el artículo uno del estatuto de autonomía tiene una dimensión y

de lo que sería el ámbito autonómico es legítimo todo anhelo que pretenda una realidad jurídico política y administrativa vasca

un ejercicio de precisión conceptual de hacer un análisis cartesiano de lo que estamos hablando

de menor entidad que lo vasco pero es por esto que le digo

es posible llevar a cabo negociaciones en el ámbito vasco en el ámbito autonómico claro naturalmente que sí

desde el punto de vista territorial o geográfico es perfectamente posible y además llevar a cabo negociaciones colectivas que aboquen a convenios de eficacia general convenios de naturaleza estatutaria es decir con eficacia erga omnes que obligan a todos

nos encontramos con que efectivamente hay una patronal que presenta unos síntomas

de no acreditar suficientemente su representatividad de estar dividida también por lo menos hasta donde a mi me llega en bizkaia por ejemplo en el sector del comercio hay dos asociaciones diferentes no siempre coincidentes en gipuzkoa tampoco hay siempre

por lo tanto nos encontramos con una patronal que tampoco tiene criterios unánimes pero claro respecto de lo que es

no encontramos por ejemplo con lo que decía

no hace mucho tiempo estamos hablando del veintidós diez dos mil catorce el señor joseba villareal que decía

o más bien el único eficaz para hacer frente a la reforma laboral sonlos convenios de empresa citas tan lapidarias y es cátedra luego pues en fin

con estas apelaciones a la negociación colectiva porque es verdad la negociación colectiva no siempre da como fruto el alumbramiento de un convenio

esa idea de la confrontación llevarla al terreno dialéctico y llevarlo a las mesas de negociación

es verdad que los convenios estatales plantean incrementos salariales inferiores a los que plantean los convenios colectivos

eso es así sin embargo también es verdad que cada vez es mayor el número de trabajadores que se tienen que acoger a un convenio estatal porque no tienen un convenio que les resulte de aplicación en el ámbito autonómico y por lo tanto esa actitud

los convenios colectivos para favorecer la negociación empresa por empresa claro que trae todo esto

pero eso de echar siempre las culpas al prójimo la reforma laboral la patronal sí sí de acuerdo pero qué pasa que aquí los padrinos de esta propuesta

y creo que cuando en el ejercicio libérrimo de la actividad sindical siempre fronteriza con lo político y además legítimo también

se tiene que estar expuesto y sujeto a la necesaria crítica y en este caso una crítica bien fácil porque aquí la coherencia brilla por su ausencia y no es una incoherencia fruto de la falta de análisis no

fruto de un análisis muy calculado que persigue legítimamente también una hegemonía sindical pero hombre sopas y sorber no si hablamos de pactos de empresa hablamos de pactos de empresa pero eso efectivamente está vaciando de contenido la negociación colectiva por sectores

una defensa del derecho de los trabajadores en el nivel colectivo y es por esa razón señora arrondo no es porque estemos en desacuerdo con esa idea de tal manera que la transacción que nosotros hemos alcanzado con el partido nacionalista y a ver si la encuentro

pues no dice nada diferente a lo que ustedes plantean en esencia

pero sí dice que el parlamento vasco muestre su compromiso con la negociación colectiva en el marco que más favorezca porque yo estoy seguro que a los trabajadores

entre un convenio estatal y un convenio digamos vasco lo que preguntarán será qué salarios contempla cada uno y cuál es la jornada anual que tenemos y aquel que más me convenga

a sumar yo creo que cualquier trabajador está en condiciones de echar mano de aquel convenio que mejor proteja sus derechos con independencia de dónde se origine o dónde nazca yo creo que esto es

condiciones laborales o derechos o mejores condiciones retributivas yo creo que eso no ocurre de tal manera

esto me lleva finalmente a preguntarme en voz alta alguien de los aquí presentes yo desde luego no lo creo cree que

estaría en condiciones a día de hoy de llevar a cabo negociaciones colectivas con la patronal

ya me gustaría que esa mayoría sindical que representa tuviera digamos una mayor proyección en el ámbito de la negociación colectiva

legítimamente por supuesto todos los planteamientos que considere oportunos pero que haga lo posible que contribuya que coadyuve a lograr convenios que protejan al mayor número de trabajadores verá allí donde ela tiene mayor representación gipuzkoa por ejemplo es donde menos

en navarra por ejemplo que ela no es mayoría sindical el noventa por ciento de los trabajadores tienen cobertura por convenio en euskadi sabe cuántos el cuarenta por ciento

estas realidades no son frutos de la casualidad son fruto de una estrategia que tiene consecuencias de las que además ni siquiera se quieren hacer cargo

eso políticamente para aquellos que quieren hacer política es inaceptable y tiene la lógica crítica y el lógico reproche que es de lo que venimos a hablar nada más

muchas gracias señora presidenta y desde el escaño para anunciar que el grupo popular

para mostrar también nuestro compromiso con el marco de negociación colectiva en el sector comercial en concreto con los convenios de comercio provinciales y desde luego para trasmitir la necesidad en nuestra opinión de apostar por el diálogo

para alcanzar acuerdos en el ámbito comercial desde luego nosotros queremos que no haya posibilidad de efectivamente competencia desleal necesitamos proteger al pequeño comercio al comercio minorista y que

que todo esto se pueda hacer en aras a la mejora de las condiciones

el parlamento vasco muestra su compromiso con la negociación colectiva

solo hacen falta interlocutores que quieran llevar a cabo

de los que usted habla solo hace falta eso lo que nosotros no podemos hacer

como cree conveniente nosotros tengamos que decir cómo tienen que negociar nosotros creemos que efectivamente tienen que mejorar las condiciones de los trabajadores se tiene que homologar a los que mejores condiciones tienen que los convenios estatales no

convenios que se registran en la comunidad autónoma cierto pero para llevar a cabo esa homologación

interlocutores con ganas de llevar a término ese tipo de acuerdos nosotros no podemos obligar a las partes que intervienen en esas negociaciones a que lo hagan

cuando nosotros es nuestra enmienda decíamos que instábamos al gobierno vasco a que exhortara

a que muestren su compromiso con el territorio adhiriéndose a los convenios provinciales es decir ni siquiera hace falta una negociación con lograr que esas

y nos parecía oportuno apelar un poco a ese compromiso porque hasta a veces en la publicidad de estas empresas

pero como tampoco estamos tan apegados a nuestras tesis y tenemos siempre voluntad de consenso y de acuerdo efectivamente hemos tratado de ver primero con ustedes como proponentes también con el grupo nacionalista si podíamos llevar a cabo algún tipo de acuerdo y el acuerdo al que llegamos no difiere en absoluto de cual es la esencia y el propósito como le he dicho anteriormente de su propuesta porque de lo que se trata es de que esos convenios de grandes almacenes se traduzcan en

que lo planteamos en el ámbito de la mesa de diálogo social bien podía ser en otro ámbito pero es que realmente ese es una mesa un lugar de encuentro donde realmente habría que tratar tantas cosas verdad

la transacción a la que hemos llegado en los términos en los que está aunque

su literatura no les de satisfacción no difiere para nada

de lograr si puede ser en el ámbito del diálogo social o de cualquier otro ámbito de encuentro para interlocutores económicos y sociales que se consiga que efectivamente todos esos trabajadores que usted cita esas grandes empresas pues muestren efectivamente que

elementos y factores macroeconómicos y que efectivamente su compromiso con el territorio significa que no va a haber un trato digamos peor para sus trabajadores que el que puede tener otros trabajadores del comercio del comercio minorista y como se ha dicho eso es

por lo tanto como le digo señora arrondo la transacción a la que llegamos no es una transacción que esté alejada de los planteamientos que ustedes hacen lo que pasa es que está formulada en unos términos que bueno en fin aquí cada uno cultiva la semántica que cree oportuna y a lo mejor la que aquí

a sus propósitos pero en cuanto a sus contenidos en cuanto al alcance que pretende y la voluntad que quiere digamos auspiciar

corroborar lo que acaba de decir el señor itxaso creo que en esencia no tenemos

pero sí que me va a permitir que le aclare un par de puntos nosotros no hablamos de mesa de una mesa

nos parece importante y por eso lo hemos introducido el valor del diálogo social nos parece totalmente inconcebible que para el avance de una sociedad

de las condiciones de los trabajadores se renuncie o se de la espalda al diálogo social por eso porque nos parece un valor fundamental y que también tiene que estar

e interiorizado por la sociedad vasca nos ha parecido muy importante el introducirlo y en segundo lugar para qué queremos esto pues queremos

socioeconómica de donde se sitúan en el territorio en el que se sitúan en euskadi apliquen los convenios provinciales del comercio

apliquen los convenios provinciales primero tienen que existir los provinciales y es por eso que hacemos en primer lugar un llamamiento

para negociar y acordar los convenios provinciales del comercio

lo puedan aplicar nosotros pensamos sinceramente que esa es la mejor manera

y las cosas por su orden con voluntad de diálogo de negociación y de acuerdo es insisto el mejor favor que podemos hacer a esas